sabemos que el gobierno vasco ha mantenido abiertas todas las vías de negociación y mediación con los representantes de los y las trabajadoras de lanbide y entendemos

en la decisión de desconvocar las mencionadas huelgas por ello

para el buen funcionamiento de lanbide además el departamento tenía otro frente abierto con los trabajadores y trabajadoras del servicio de teleasistencia

y tenían anunciadas más jornadas de paro que afortunadamente

la semana pasada nos alegramos al tener conocimiento de la desconvocatoria de huelga porque en este caso también afecta a personas de gran vulnerabilidad entre las que se encuentran las personas de edad más avanzada

en el caso de la teleasistencia en estos momentos los paros están efectivamente desconvocados porque en las diversas reuniones mantenidas y finalmente

se alcanzaron acuerdos mínimos que favorecieron la desconvocatoria de dichos paros el compromiso adquirido ratificado después por la asamblea de trabajadores

las jornadas la seguridad la salud la estabilidad de la plantilla y algunas otras cuestiones en cualquier caso todavía hay materias que acordar que se abordarán

de relaciones laborales por otro lado un seno correcto para plantear este tipo de conflictos y tratar de resolverlos lanbide es un instrumento capital de la ejecución de las políticas de empleo y un elemento más que relevante en favorecer la cohesión social de nuestra sociedad

durante toda la legislatura quiero remarcarlo representantes de este gobierno han mantenido numerosas reuniones con la representación de los trabajadores

a lanbide de una necesaria relación de puestos de trabajo que convirtiera este organismo autónomo en un instrumento eficaz en la gestión de las políticas

las conversaciones y contactos que se han mantenido antes y después de las jornadas de paro no han renunciado nunca al diálogo y a la negociación en ningún momento y así en la última de las reuniones habidas el pasado dieciocho de mayo una reunión convocada para hablar de retribuciones de niveles de valoración

de distribución espacial de la plantilla y otras cuestiones como consecuencia de la misma las centrales desconvocaron los paros previstos

de escucha de diálogo y de encuentro que se está teniendo desde el gobierno vasco ante los distintos conflictos o problemas que se presentan

que nos afecta a todos los miembros del gobierno en nuestra voluntad

que sean posibles en los conflictos que se están o que se puedan plantear en el ámbito de la administración eskerrik asko eskerrik asko

egin izan dugun bezala el objetivo es claro analizar y mejorar nuestro sistema educativo ustedes mientras tanto pueden seguir malgastando sus fuerzas

con el fin de mejorar nuestro sistema educativo por ello insistimos en la importancia de estas evaluaciones

son de gran ayuda en el proceso de mejora continua de nuestro sistema educativo por ello seguiremos adelante con el proceso establecido y apelamos a la responsabilidad de los centros y de las familias no son un adelanto de las reválidas en contra de lo que se está transmitiendo a las familias esta consejera y este gobierno

familiak nahasten informazio erratua eskaintzen zuen interesen arabera señora arrondo ahora que estamos en un momento de reflexión

quizás la utilización política que se está haciendo de este punto debiera ser también motivo de reflexión por su parte en todo caso este departamento continuará con el proceso previamente establecido

y se diseñará la evaluación diagnóstica del próximo curso en colaboración con los propios centros ekarpen garaia bukatuta dago orain heziberri garatzeko eta modu arduratsuan

consejero egun on denoi señor consejero en algunas ocasiones estoy de acuerdo con usted coincidimos

directa a los pacientes y los dos hemos tenido la oportunidad de la gestión sanitaria por eso estoy de acuerdo con usted cuando dice que garantizará

siguiendo criterios clínicos dejando que sean los especialistas de digestivo y de enfermedades infecciosas

determinen ese tratamiento eso es lo que usted dijo el pasado mes de marzo en una entrevista que está recogida en la página web oficial del gobierno

está haciendo dos meses después no es eso ni garantiza a todos el tratamiento con los modernos y eficaces fármacos disponibles ni se siguen los criterios clínicos se siguen criterios de gestión sanitaria

para replicar a los pacientes que le reclamaban que se les atienda como en el resto de las comunidades autónomas según sus propias explicaciones ahora se atiende

lo que ustedes llaman f cuatro pero según nos dicen los propios afectados ni siquiera el colectivo completo de los enfermos más graves está recibiendo el tratamiento

ni clínica ni como ustedes dicen económica sino de pura gestión clínica para no aplicar estos tratamientos a los pacientes

curan a los enfermos y evitan que los enfermos empeoren y tengan que seguir en tratamiento farmacológico qué pasa no tiene usted dinero por eso lo que le digo desde el acuerdo entre lo que usted dice y el desacuerdo con lo que usted le pregunto en qué momento va a aplicar las recomendaciones aprobadas por este mismo gobierno en el consejo interterritorial

en primer lugar quiero enviar un mensaje de solidaridad y tranquilidad

en euskadi y para alejar este debate de la utilización política decir alto y claro que desde el departamento de salud y desde osakidetza vamos a seguir esta enfermedad como un problema de salud vamos a seguir velando por las personas afectadas y también por el sistema sanitario público en su conjunto

ha tratado y trata adecuadamente a todas las personas que sufren cualquier enfermedad y a los pacientes con hepatopatía crónica

en relación con la estrategia de recomendaciones acordadas en el consejo interterritorial para atender a los pacientes

que como sabe desde el inicio estamos de acuerdo con los criterios clínicos con todos en su conjunto esos mismos criterios son los que se están aplicando indicaciones clínicas priorización en función de la fibrosis este humilde consejero no ha inventado nada de f cuatro efe hiru efe bi efe bat efe zero

fármacos y también con los plazos definidos para tratar a todos los pacientes jarraibide horiekin bat etorriz lan egiten dugu gaixo guztiei tratamendua

el ministerio de sanidad no ha dado a conocer memoria económica alguna de la estrategia

de poner en marcha un plan especial de financiación tampoco se conoce ningún detalle de los acuerdos alcanzados entre el ministerio

para la gestión y la sostenibilidad de nuestro sistema público de salud pese a esto se están tratando de manera escalonada a todos los pacientes y además estamos pagando los tratamientos dispensados a través del presupuesto del gobierno vasco

quieren que usted les dé el tratamiento que ellos demandan y que les atienda no solo a los más graves

y que mueran como se está haciendo en el resto de las comunidades autónomas yo le admito claro que usted tenga una estrategia distinta discreparé porque

porque entonces es cuando el parlamento entra y la responsabilidad de los parlamentarios en controlar su tarea porque su departamento se sumó

pero su forma de ejecutar es absolutamente divergente del resto de las comunidades autónomas estamos a la cola según nos comentan los propios afectados miren ustedes todas las comunidades autónomas tratan a los menos graves a los que están un poco más graves y a los muy graves y aquí a los muy graves y no a todos porque claro usted dice que de forma escalonada pero qué es eso

se permitió criticar a los enfermos por su ideología política lo último que hubiéramos podido esperar de un consejero es que en lugar de recibir a un enfermo y ver solo a un enfermo vea a un competidor ideológicamente diferente señor consejero no estuvo usted afortunado en eso en fin lo que le volvemos a decir es que usted tiene una responsabilidad con los enfermos

no solo con los muy graves con todos los demás también eskerrik asko roncal andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

gai nahiz diru baliabideen arloan estamos ante una buena noticia una enfermedad grave

dispone de un nuevo tratamiento más eficaz que va a beneficiar a personas enfermas

están dando la respuesta adecuada que es el tratamiento escalonadamente

se trata por prioridad no es como en la pescadería el primero que llega coge el número desde luego no estamos ante un problema político

en euskadi se van a tratar todos los pacientes afectados por hepatopatía crónica por el virus de la hepatitis cien y además no se va a poner en riesgo la financiación futura

osasun sailburua la verdad es que no entendemos señor consejero qué está pasando con este tema y dónde está el problema porque usted en esta tribuna dice que el problema no es económico quisiera que nos aclarara desde luego al grupo popular dónde está el problema mire la realidad

están siendo discriminados los enfermos afectados por hepatitis cien en euskadi están siendo discriminados respecto a los pacientes de otras comunidades autónomas en euskadi

en euskadi respecto a pacientes de otras comunidades autónomas en euskadi la realidad es que no se están administrando los nuevos tratamientos en muchos casos

en esa fase a la que se supone que se tenían que estar dando a los administrados estos tratamientos

y los calificados como f dos y f tres tienen que esperar por lo menos al dos mil dieciséis en el mejor de los casos cosa que no está pasando en otras comunidades

están claramente en peores condiciones en atención sanitaria que los enfermos del resto de españa y la realidad que estamos conociendo todos los días casos que nos están llegando es que incluso enfermos calificados como graves en la fase más avanzada f cuatro

no lo hacen porque no tienen autorización menos mal señor consejero que se estaban siguiendo criterios clínicos ahí están los criterios clínicos de los médicos que prescribirían estos nuevos tratamientos a los enfermos en fase más avanzada incluso alguno de ellos como estamos conociendo casos que no están llamando desde luego a este grupo

por qué y por qué razones no se les está dando incluso a estos enfermos los medicamentos más avanzados y desde luego la actitud de este gobierno de negar estos tratamientos está perjudicando claramente a los enfermos de hepatitis cien en euskadi

o ver como empeora su situación o puede agravar su situación mientras que conocen que pacientes de otras comunidades autónomas pacientes de logroño de burgos y madrid tienen los tratamientos demora que aquí les están negando señor consejero por lo tanto no nos diga que se está abordando este problema desde una perspectiva desde la salud porque si no

en otras comunidades autónomas por eso le preguntamos señor consejero qué valoración hace acerca de que otras comunidades autónomas vayan por delante

egun on berriro repase señora garrido lo que acaba de decir usted aquí porque ha hecho un papelón en euskadi

contamos con un sistema sanitario universal público y de calidad que siempre

y esto pese a las políticas impulsadas por su partido desde el gobierno de madrid esta legislatura aplicadas por urgencia y como legislación básica los inmigrantes también tienen hepatitis osakidetza sigue siendo un referente para los vascos y vascas

nos sentimos muy orgullosos de ello lo hemos dicho

datos señora garrido que avalan los hechos en euskadi estamos tratando a las personas afectadas por hepatitis cien y vamos a tratar a todas las personas afectadas datos

euskadi fue de las primeras comunidades que a partir del primer semestre del año pasado

los nuevos medicamentos mientras el ministerio de sanidad dirigido por la señora ana mato del partido popular no terminaba de aprobar la autorización de uso de estos fármacos en el sistema de salud desde enero a noviembre para autorizar el uso del sofosbuvir

está tratando a todas las personas afectadas de hepatitis cien siguiendo los criterios médicos de la denominada

establecidos por un comité de expertos en la que hemos participado activamente

que no se utilizan los nuevos medicamentos que hay inequidades entre territorios y centros

porque usted sabe también como yo que hay pacientes antes de ayer

y que le ha dicho el médico que no tiene autorización para darle el tratamiento y que vuelva usted mañana y le van a dar una nueva cita por lo tanto no falte a la verdad en esta tribuna cuando usted sabe que a pacientes calificados

le digo qué paciente es porque claro usted está aquí diciendo una cosa en esta tribuna pero la realidad en euskadi es que hay pacientes calificados como f cuatro ya no estoy hablando de los pacientes calificados como f dos y f tres que en otras comunidades se les está dando el tratamiento y en euskadi no sino pacientes calificados como f cuatro que se les está diciendo vuelva usted mañana y eso es lo que está pasando aquí y usted como consejero tendrá una responsabilidad en eso

y mire no me hable de la señora mato hábleme de lo que ha hecho el nuevo ministro de sanidad

por todas las comunidades autónomas incluida el país vasco donde había

en ese grupo de trabajo y ustedes están incumpliendo

que otras comunidades autónomas están llevando a cabo ustedes son la única comunidad autónoma que no están poniendo en marcha esos criterios ustedes sabrán que no
usted tendrá que aclarar y tendrá que aclarar a los enfermos a esos enfermos que están viendo cómo eskerrik asko garrido andrea eskerrik asko

ni nosotros ni ninguna comunidad ni ningún país puede tratar todos los pacientes que en este momento tienen hepatitis cien el primer día lo hacemos pese a que desde el ministerio de sanidad dirigido por su ministro alonso la estrategia de abordaje a la hepatitis cien aprobada continua siendo provisional

el ministerio no ha contestado a las alegaciones de las comunidades no tiene memoria económica se desconoce el modelo de financiación se ha suspendido sine die la reunión con las consejerías de hacienda no tenemos información de los acuerdos

se invaden nuestras competencias de negociación de precios en los concursos públicos de adquisición de fármacos hospitalarios pero mire el gobierno vasco va a continuar asumiendo sus obligaciones gobernar para las personas

datos señora garrido datos que demuestran que gestionamos los recursos públicos con rigor equidad y transparencia se han tratado ya en euskadi más de setecientos personas

y somos el cinco por ciento de la población del estado pida datos y saque conclusiones y vamos a seguir tratando

escalonadamente y además estamos pagando los costes de los medicamentos con el presupuesto del gobierno vasco velando por la sostenibilidad del sistema sanitario público algo que parece que ha dejado de ser normal en comunidades gobernadas por ustedes hasieratik esan genuen eta datuek erakusten duten bezala

muchas gracias señora presidenta buenos días a todas y a todos señoras y señores consejeros señor lehendakari el pasado

transaccional firmada entre el grupo socialista y upyd que fue además apoyada por el partido popular y por el propio partido nacionalista vasco todos apoyaron esta transaccional

esta transaccional lo que pedía era al departamento de seguridad del gobierno vasco la restricción inmediata y sustitución definitiva de las escopetas lanza pelotas y de las pelotas de goma por otros medios antidisturbios menos dañinos para las personas que permitan además

realizar correcta y eficazmente su labor también se instó al departamento a que dote a la ertzaintza de nuevos materiales antidisturbios y a capacitar a los agentes en su utilización

de todos los medios e instrumentos necesarios para garantizar su seguridad

como ante el desarrollo de actos violentos sin embargo el día seis

en una entrevista en radio euskadi rechazó suprimir las pelotas de goma porque decía hay que estar preparados y añadió yo no soy partidario de erradicar

si el departamento va a cumplir el mandato parlamentario aprobado por el partido nacionalista vasco el partido socialista de euskadi el partido popular y upyd

entendieron lo que se pedía en esa transaccional si ustedes entendieron ese mandato parlamentario y segunda duda si efectivamente ustedes van a cumplir ese mandato parlamentario gracias

directo y claro en su exposición de argumentos

que requieren de una actuación y de un control policial es así en todas las policías democráticas de europa y en todas las policías del mundo

situaciones y actuaciones policiales en desórdenes públicos afortunadamente aquí en euskadi este tipo de circunstancias están siendo

pasado cercano pero también la ertzaintza tiene el cometido

a situaciones complejas de seguridad y de orden público como bien sabe cuando estas se producen es obligación de la ertzaintza que se cumpla la ley velar porque agreda a nadie que nadie destruya bienes públicos o privados que nadie imponga sus exigencias por encima de los derechos y las libertades de los demás pero su intervención señor maneiro odia intencionadamente

que puso de manifiesto la necesaria reflexión no solamente sobre los materiales en sí mismo que utiliza la

que se debe hacer de él que eso es lo importante y en este sentido busca analiza y selecciona nuevos materiales pero no solamente eso también trabaja en nuevas técnicas en nuevas tácticas y en nuevos sistemas de pero sobre todo prevé y previene situaciones complejas de desorden público para tratar de garantizar mejor la seguridad de la ciudadanía y de los propios agentes

transaccional que firmó el parlamento sí en ese camino estamos eskerrik asko beltrán de heredia andrea maneiro jauna zurea da hitza

decir que él no es partidario de suprimir las pelotas de goma por eso y puesto que se aprobó una transaccional pidiéndolo yo le he preguntado a usted si efectivamente va a cumplir

esperamos que así sea porque en otros muchos casos otros mandatos parlamentarios no han sido cumplidos por este gobierno por lo tanto el mandato parlamentario entiendo que es claro se pide la sustitución definitiva de las pelotas de goma y por lo tanto esperamos que cuanto antes se cumpla y sea efectivo y así se haga

en aquel mandato y no lo incluimos por una sencilla razón que creo que debe ser explicada en nuestra opinión no tenía sentido pedir la prohibición de este material porque esto podría significar algo así como que los propios ertzainas tendrían

pero desde el gobierno desde el departamento se prohibiera utilizarlos por eso no utilizamos esa expresión de prohibir lo que se trata es que el departamento entregue a los ertzainas un material apropiado distinto al de

pelotas de goma un material eficaz efectivamente y que garantice la seguridad de todos los ciudadanos por supuesto también la seguridad de los propios

efectivamente hay grupos o actuaciones violentas

debe responder lo que pedimos es que lo haga con el material más eficaz posible no décimos por lo tanto que dejen de utilizarse las pelotas de goma

sino que aunque haya episodios de violencia no se utilicen las pelotas de goma por lo tanto el mandato parlamentario es claro

y lo que nosotros pedimos es que el departamento efectivamente lo cumpla ya cuanto antes gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

del conjunto de la ciudadanía y también la de los propios agentes la selección de los lanza bolas actuales fue un proceso

es más incluso se han aplicado mejoras durante su uso hemos necesitado también muchos recursos materiales y organizativos para dar la formación y siempre con la misma voluntad

con los medios más adecuados posibles los lanza pelotas en fin los medios como decía más eficaces situaciones difíciles de orden público medios materiales que se utilicen con conocimientos profesionales fundados conocimientos profesionales profundos

producirse y lo está y lo está por eso incidimos tanto en la

hoy por hoy no es posible responder a situaciones críticas sin ningún tipo material policial eso es claro y creo que todos estamos de acuerdo ahora bien los lanzapelotas se han eliminado de las comisarías se ha restringido su uso

y solamente en situaciones excepcionales y además bajo órdenes específicas de sus superiores por tanto todo esto queda recogido en una instrucción policial y como le decía este es el acuerdo que se firmó en la transaccional del pasado día dieciséis

eta esaten du el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en el periodo de consultas del proyecto de campaña sísmica terrestre

del permiso de investigación de hidrocarburos géminis informe de las condiciones límites y medidas que considere necesarias para garantizar la máxima protección ambiental

el parlamento vasco insta a la diputación foral de bizkaia a que de conformidad con la legislación aplicable

de verdad está interpelando al gobierno con una pregunta pero realmente lo que usted ha hecho en esta tribuna es interpelar al grupo parlamentario lleve a la ponencia donde se encuentra gracias por todas las explicaciones de las enmiendas que han presentado ustedes y por explicarnos aquí en lugar de en la ponencia donde se está debatiendo lo que ustedes han presentado pues gracias además nos ha explicado lo que ha presentado el grupo parlamentario creo que ellos lo explicarán suficientemente bien cuando les corresponda y desde luego

este gobierno tomará las decisiones oportunas cuando se haya finalizado

todavía tiene un camino y veremos lo que ocurre todavía ustedes tienen tiempo de debatir y por favor no venga a interpelar al grupo parlamentario cuando lo que corresponde es interpelar al gobierno y sobre todo

y usted presenta aquí en tribuna algo que no tiene nada que ver con la interpelación por escrito eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea maeztu jauna zurea da hitza

zer esaten zuen ante el debate existente en el parlamento para prohibir la técnica del fracking

corresponde al gobierno vasco sin embargo ha anunciado que de momento seguirán investigando porque les parece imprescindible

sí gracias presidenta señor consejero hace ya dos años

para instar al gobierno vasco a presentar en este parlamento un proyecto de ley de transparencia que recogiera una serie de principios que nosotros consideramos fundamentales y que son

absolutamente fundamentales el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona el derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas a todos los poderes del estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas y o reciban dinero público

del mismo el derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada recibida o en posesión de las entidades públicas sin importar como esté almacenada realizar solicitudes debe ser sencillo rápido y gratuito los funcionarios tienen la obligación a los solicitantes toda la información en poder de las administraciones de todos los poderes del estado y de todas aquellas entidades privadas que ejerzan funciones públicas debe ser

excepcional las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso

realizadas las entidades públicas a iniciativa propia deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario una solicitud el derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente el gobierno será el principal encargado de realizar labores de promoción del derecho garantizando y promoviendo el conocimiento y uso de dicho derecho se establecerán en la ley sanciones

legislativo pedimos por lo tanto hace ya dos años una ley de transparencia propia e independiente es decir una ley diferenciada y en concreto

y discipline el quehacer de la administración pública vasca una ley desde luego que fuera más allá que la ley nacional que ya criticamos en el congreso de los diputados

insuficiente en la justificación de aquella iniciativa decíamos que los ciudadanos necesitan acceder a toda aquella información que les permita conocer y evaluar con objetividad

tal información debe considerarse como propiedad de los ciudadanos que las administraciones públicas y el sector público han de generar de manera activa la información relevante para la comprensión de su actividad y deben hacerla accesible

que toda información registrada de cualquier forma elaborada o recibida y en posesión de las autoridades es pública de modo que solo se puede limitar el acceso a esta información

legalmente tasados que todas las personas tienen derecho a solicitar cualquier información a todas las administraciones e instituciones públicas sin tener que explicar para qué la quieren

en un plazo breve y en un formato claro y comprensible que un efecto importante fundamental de las medidas de transparencia de la gestión

el despilfarro y la mala gestión que cualquier entidad o persona que se beneficie de ayudas públicas debe dar cuenta igualmente pública del uso de esas ayudas y a partir de ahí hace ya dos años pedíamos que este parlamento instara al gobierno vasco a presentar en el plazo máximo de seis meses de la aprobación de aquella iniciativa

de transparencia y proponíamos también instar al gobierno vasco al desarrollo de un portal de transparencia que diera cabida a toda la información relativa a la administración donde como mínimo quedaran reflejadas las retribuciones e indemnizaciones

altos cargos y miembros del gobierno vasco el registro de actividades

altos cargos y miembros del gobierno la totalidad de la contratación de la administración pública vasca las listas de contratación temporal del personal las concesiones administrativas el inventario actualizado de los procedimientos administrativos las resoluciones administrativas

el gasto público realizado en campañas institucionales y sus destinatarios todo esto pedíamos en aquella iniciativa de hace dos años por lo tanto exigencias evidentemente máximas para que pudieran ser llevadas a cabo cuanto antes y puestas en marcha por este gobierno

pedíamos que se incluyera dentro de ese portal de transparencia un registro de contratos un registro de adjudicatarios un registro de convenios de colaboración y un registro de subvenciones finalmente el gobierno vasco decidió presentar

de la administración pública vasca donde se incluyó los asuntos relacionados con la participación la transparencia y el acceso a la información es evidente

y así ha sido trasladado por la mayoría de grupos de este parlamento que ese proyecto se quedó corto y muy lejos de los principios que desde luego

sigue defendiendo el proyecto remitido por el gobierno vasco prefirió hacer un seguidismo absoluto de la ley nacional de transparencia una ley nacional de transparencia que nosotros criticamos en su momento por ser claramente insuficiente en lugar de utilizar las competencias de este gobierno para ir más allá

fue hacer un seguidismo absoluto de esa ley nacional de transparencia al tomar como modelo una ley que no supo adaptarse a los nuevos tiempos este proyecto de ley por lo tanto nacía muy limitado

de que no se previera un régimen de sanciones jurídicas pero es que además la primera parte del proyecto de ley aquella que hacía referencia a la organización de la administración pública vasca

mejorable no intentaba simplificar clarificar reducir y modernizar el entramado institucional vasco era un proyecto de ley farragoso era un proyecto de ley que renunciaba a regular y ordenar los sectores públicos de todas las administraciones vascas

y los entes locales no se veía en ese proyecto ni se vislumbraba siquiera una estrategia de simplificación y reducción del entramado administrativo o de control

de gestión por lo tanto era un proyecto de ley que se quedaba corto y que era poco ambicioso que no cumplía los principios mínimos que una ley de transparencia debería cumplir que renunciaba a regular y ordenar el sector público de los entes forales y el de los entes locales

la ley nacional de transparencia no incluía tampoco un régimen sancionador un proyecto que renunciaba por lo tanto a una transparencia radical y a limar

de esta cámara y como consecuencia de ello se presentaron tres enmiendas de totalidad cuyo argumentario debo decir que es bastante semejante

hubo una coincidencia bastante general hubo puntos al menos en común que veníamos en fin a compartir grupos claramente distintos a partir de ese momento y esto es algo que ciertamente me llama la atención el gobierno retiró el proyecto y esto es algo ciertamente de verdad se lo digo que me dejó perplejo es decir el gobierno no hizo absolutamente nada o al menos no hizo todo lo posible para

lo tomará en consideración y a partir de ahí pudieran debatirse las enmiendas no hizo nada el gobierno no se puso en contacto con upyd

en ese momento y en ese tema el voto de upyd podía ser absolutamente fundamental el gobierno vasco decidió no hablar con los grupos parlamentarios

pasar los días y finalmente decidió retirar este proyecto y no solo eso sino que además acusó a los grupos electoralismo todo esto me lleva a pensar por un lado lo que ya vimos que era un proyecto de ley claramente insuficiente muy mejorable

me lleva a pensar que el gobierno no quería que se aprobara ese proyecto de ley ya digo el voto de upyd podía ser decisivo

de acercamiento ningún tipo de negociación y por cierto a los días nos enteramos cuando definitivamente se retiró este proyecto

que usted dijo en una rueda de prensa esa misma mañana que el gobierno estaba dispuesto a aprobar trescientos enmiendas parciales y el resto de grupos sin saber nada de eso en fin qué es lo que va a hacer este gobierno en relación a este proyecto de ley cuándo va a volver a presentarlo qué contenido va a tener

egun on guztioi señor maneiro me ha parecido advertir en su intervención tres partes claramente diferenciadas una la habitual en sus intervenciones

lógica en una formación política de oposición de reproches de grueso calibre

en los contratos se repiten unas mismas cláusulas de modo sistemático les llamamos las generales de ley después cada contrato recoge las cláusulas especificas aplicables

por tanto las tomó sencillamente como una cláusula estilo sin más que son imprescindibles en sus intervenciones esta vez

acusado de incapacidad para asumir la posición de minoría que tenemos en el parlamento

incapacidad que yo creo que no tiene ningún fundamento para reprochárnoslo porque somos perfectamente conscientes de que estamos el gobierno está apoyado por un grupo parlamentario

sus desvelos y sus esfuerzos para defender las posiciones del gobierno y su compromiso con los planteamientos del ejecutivo

ahora bien de la misma manera que nosotros tenemos que asumir esa situación de minoría que tenemos en el parlamento le sugiero que usted también sea consecuente con esto

que afirme aquí tajantemente como lo ha hecho que el gobierno no hizo nada no negoció con ningún grupo parlamentario

porque no hablamos con usted o no negociamos con usted es mucho pretender

pretenda transmitir aquí la idea de que las mayorías que pudieran conformarse el día

dependían de su voto es mucho pretender asuma también usted su posición

a conformar o a impedir la conformación de mayorías pero no dé por supuesto la hipótesis de que se produjera esa enmienda a la totalidad y ese pleno por el que usted suspiraba su voto fuera a ser decisivo es decir que había otras formaciones políticas que no habían puesto enmiendas a la totalidad pero nada impedía que apoyarán las que se estaban registrando su voto por tanto tiene

más allá del capítulo de reproches ha hecho una referencia retrospectiva a lo que son los antecedentes de

unos antecedentes que no se remontan a la resolución que se adoptó hace dos años esa a la que usted ha hecho referencia se remontan mucho más atrás en la pasada legislatura

todas las cuestiones relativas a la organización funcionamiento y régimen del sector público de la comunidad autónoma hubo debates que concluyeron todos en marzo del año dos mil once cuando la cámara aprobó una resolución instando al gobierno a presentar un proyecto de ley

de presentarse y de registrarse en la cámara por tanto

más lejos en cualquier caso el compromiso de este gobierno con la trasparencia es incuestionable algunas de las cuestiones y los

están siendo objeto de una aplicación rigurosa y sistemática por parte del ejecutivo

está en perfecto funcionamiento y ahí puede usted consultar

todos los contratos que están siendo objeto de ejecución en este momento por parte del gobierno todos hay no solamente

el revascon el registro vasco de contratos da información exhaustiva y actualizada fíjese de todos los contratos analícelos de mi departamento de los que están

exhaustiva bastante avanzada que se puede mejorar no lo voy a poner en duda que se puede avanzar mucho más en ese y en otros ámbitos no lo voy a poner en duda pero fíjese el único indicador

los compromisos de las administraciones públicas con la transparencia que son las auditorias

nos ha dado la máxima puntuación por tanto en fin entre los indicadores de

y su opinión particular en esta tribuna pues francamente yo creo que tiene más calidad objetiva

de una agencia especializada y reconocida en el ámbito internacional en esta materia bien sobre el contenido del proyecto ley sobre el contenido de las

podríamos estar haciéndolo ahora mismo en comisión si no hubiese en periodo electoral concurrido

proyecto de ley usted yo entiendo que podrá intentar convencerme a mí de que todo fue casualidad fíjese ese proyecto de ley se aprobó por parte del gobierno el dieciséis de septiembre del año pasado se registró en la cámara el seis de octubre del año pasado yo mismo comparecí

el veintiséis de noviembre y estuve casi tres horas departiendo sobre los contenidos del proyecto de ley por cierto usted en aquella comisión no estaba sí sí la vería pero no estaba para expresar sus puntos de vista sus discrepancias tal el resto de los grupos parlamentarios estaba allá

no se fijaron posiciones nadie marcó líneas rojas nadie dijo yo creo que esto es insuperable y estoy radicalmente en desacuerdo en esto me ofrecí a continuar dialogando y manteniendo contactos con todos los grupos parlamentarios en relación con los contenidos de la ley y a escuchar sus aportaciones porque mi planteamiento fue francamente abierto en aquella posición

en el mes de diciembre se abrió el periodo de presentación de enmiendas los plazos de presentación de enmiendas fueron sucesivamente hasta que súbitamente los días veintitrés y veinticuatro de marzo

después de varios meses de incomunicación de que los grupos parlamentarios no atendieron en absoluto a la invitación del gobierno para hacer sus aportaciones sus alegaciones expresar sus puntos de vista

la semana previa a la semana santa las tres enmiendas a la totalidad y con intención de que el pleno de totalidad se celebrara la

este parlamento tiene una actividad intensivísima tanto en la semana

la previa a la semana santa se presentan las tres enmiendas de totalidad con intención de debatirlas en la semana inmediatamente posterior a la de pascua en fin el marco para poder establecer

abordar el fondo del asunto pues era amplísimo hoy podríamos estar debatiendo estas cuestiones en comisión pero las enmiendas a la totalidad presentadas en esas circunstancias lo impidieron

los contenidos de la ley y podría aceptar muchos de los contenidos que están recogidas en las enmiendas

un poco menos y había grupos parlamentarios en los que el desajuste entre el contenido de la enmienda a la totalidad y

se notaba se notaba demasiado claramente que estaban trabajando en una línea con las enmiendas parciales y de repente se encontraron con que había que registrar una a la totalidad

no tenía nada que ver con lo que recogían las parciales esto era evidente en algunos casos por tanto esa homogeneidad que usted atribuye

no era para tanto en cualquier caso sí había algún aspecto compartido por las tres por ejemplo la idea de que en lugar de una ley el contenido

es una fórmula técnica legislativa se nos decía que se imponga el modelo español que españa hay una ley para la organización y funcionamiento y otro para la de transparencia en españa tiene sentido porque la lofage

y cuando llegamos al siglo veintiuno hace falta una ley complementaría que habla de la transparencia y de la participación que no existía aquí como no hay lofage

era integrarlo todo en una misma norma jurídica era integrarlo en un mismo articulado para facilitar las cosas a efectos de la transparencia para que el operador jurídico tuviera mucha más claridad operando con una sola norma jurídica que usted operara por el modelo español tenía lógica que el partido socialista lo hiciera también tenía lógica que eh bildu dijera que el modelo español es el suyo

usted pregunta sobre lo que vamos a hacer mire yo efectivamente prometí que iba a trabajar en la elaboración de dos textos articulados

que entre también en euskadi estamos trabajando pero usted sabe que en fin el procedimiento de elaboración de disposiciones generales es largo es complicado estamos en ello como diría aznar estamos trabajando en ello

vamos a ver en cuanto al reproche de grueso calibre que caracteriza a la acción de control al gobierno por parte de upyd yo le he explicado qué tipo de ley queríamos porque ya digo que hace ya dos años defendimos una iniciativa para que este gobierno presentara cuanto antes una ley de transparencia

muy avanzados es decir ya lo defendimos en este parlamento y he hecho una comparativa en relación a qué era lo que upyd quería qué tipo de ley quería qué tipo de ley de transparencia quería y qué tipo de ley se nos trajo a este parlamento esto es lo que yo he hecho en mi primera intervención usted lo califica como reproche de grueso calibre y yo creo ha sido una intervención bastante ajustada medida

lo curioso es que usted acusa al resto de partidos políticos de bloquear la acción del gobierno o de impedir que tengamos a día de hoy

que pudiéramos estar debatiendo ya y la responsabilidad máxima de que tengamos o no una ley de transparencia o una ley de administración pública es del gobierno

por lo tanto no trate de buscar culpables si ustedes están en minoría en fin tendrán que buscar supongo yo acuerdos con el resto de partidos políticos

ayer mismo una parlamentaria del partido nacionalista vasco se puso en contacto con un servidor para hablar de la ley de adicciones me parece muy bien efectivamente así tiene que ser pero resulta que en un asunto tan fundamental como este en una ley tan

resulta que nadie se pone en contacto con upyd que somos uno sí pero que podía ser fundamental en ese debate porque se presentaron tres enmiendas de totalidad éramos treinta y ocho parlamentarios frente a treinta y siete por lo tanto es posible que el voto de upyd clave y sin embargo no se hizo ningún tipo de esfuerzo para dialogar o negociar con upyd

ningún tipo de acercamiento y además por lo que han dicho el resto de grupos cosa parecida cosa muy parecida pasó con esos grupos parlamentarios por lo que se dijo el gobierno tampoco dialogó ni con eh bildu ni tampoco con el grupo socialista ustedes sabrán por qué nos acusan de electoralismo por parte de upyd

señala que usted compareció hace algunos meses en fin esos son los plazos parlamentarios habituales que piden ampliaciones de plazo

a fondo las diferentes leyes y a partir de ahí se presentan las enmiendas eso fue lo que hizo cada uno de los grupos parlamentarios para estudiar bien la ley

poder presentar las mejores enmiendas posibles se presentan ampliaciones de plazos pero esto no puede ser una excusa queda muy feo es una excusa muy barata la responsabilidad es del gobierno

hemos estudiado a fondo la ley y consideramos que era una ley claramente mejorable presentamos la enmienda de totalidad pero en fin esperábamos una llamada

y puesto que usted dijo en esa rueda de prensa que estaba dispuesto a aceptar

enmiendas parciales de los diferentes grupos hombre lo normal habría sido que el gobierno explicara a esos grupos parlamentarios cuántas de esas enmiendas iban a ser

las enmiendas de totalidad se podían haber retirado por lo tanto yo creo que no sé si es electoralismo en todo caso electoralismo sería por parte del partido nacionalista vasco y por parte del gobierno vasco de tratar de lanzar esa imagen de que el resto de grupos no queríamos que se aprobara una determinada ley yo creo que es más bien que el gobierno vasco lo que no quiere es que se apruebe una ley de transparencia una ley de transparencia exigente una ley de transparencia que haga posible que se sepa hasta el último

y desde luego si usted repasa cuáles son los principios que nosotros defendemos desde luego esa ley que ustedes presentaron no eran en absoluto quedaba muy lejos por lo tanto lo que ustedes tienen que hacer cuanto antes es presentar una ley que recoja esos principios y desde luego si es una ley de transparencia diferenciada mucho mejor y cuanto antes porque es para una ley supuestamente del gobierno vasco que sin embargo ustedes no han podido sacar adelante por su incapacidad

señor maneiro yo coincido con usted en que mire

lo que interesa en este momento es concretar en la medida en que esto es posible

en relación con la cámara para hacer posible que antes de que concluya la legislatura la ciudadanía vasca pueda disfrutar de dos normas jurídicas ahora ya no sería una se articularan

de una manera sistemática algo que hasta la fecha no ha ocurrido la organización del sector público de la comunidad autónoma y el régimen de transparencia aplicable en euskadi en el ámbito administrativo en lo anterior efectivamente usted como

yo inevitablemente he tenido que aportar mi propia lectura seguramente las cosas que ocurren en campaña electoral son coincidencias son casualidades en mi experiencia

esta no es una cuestión a la que haya que prestar atención en este momento

efectivamente siguiendo las indicaciones expresadas en esas enmiendas no en las de totalidad sino en las parciales de la cámara está reelaborando

ambas iniciativas en un estado bastante avanzado de elaboración hemos hecho un esfuerzo de integración de muchas enmiendas parciales

lógicamente no se incorporan todos al texto porque hay unas enmiendas por mucho que insista usted en que había una planteamiento univoco en los planteamientos de los grupos parlamentarios

que consideran que el texto que remitimos a la cámara era

poco ambicioso desde el punto de vista desde la normalización lingüística del euskera y sin embargo usted defiende todo lo contrario aquí el euskera que no se hable nada viene a decir usted por lo tanto conciliar oposiciones tan contrarias pues es un poco complicado pero estamos haciendo un esfuerzo importante de incorporación

el gobierno está trabajando al máximo ritmo posible

pautas los ritmos y las exigencias formales y procedimentales que le impone una ley que está en vigor la de elaboración de disposiciones de carácter general que fue aprobada por esta cámara

las pautas recogidas ahí por lo que se refiere al fondo del asunto mire hay una diferencia entre el momento en el que se aprobó la resolución parlamentaria a la que usted ha hecho referencia y el momento actual y es que entre tanto las cortes generales del estado aprobaron una ley en diciembre del año dos mil trece

la transparencia y el buen gobierno que no es soslayable y ahí en esa norma reguladas con carácter básico muchas cuestiones

lógicamente la norma básica no impide que los umbrales de transparencia fijados en la misma se puedan superar en algunas comunidades autónomas o en otros

pero sí es cierto que hay unas limitaciones por ejemplo con respecto a los aspectos en los que

que sí son de obligada vinculación de obligado respeto por parte de todas las comunidades autónomas por ejemplo cuando la norma básica habla del inexorable respeto a la protección de datos de carácter personal y dice que la transparencia no puede penetrar en los datos de carácter personal porque no son datos de la ciudadanía sino que son datos que obran en manos de registros públicos pero que pertenecen a cada ciudadano estos aspectos necesariamente hay que respetarlos que se puede limitar el acceso a la información por parte de la ciudadanía cuando haya en juego elementos vinculados con la seguridad pública con la investigación de los delitos y demás hay límites que hay que respetar por tanto

pero con ese límite insisto estamos ya trabajando en el texto estamos trabajando con la máxima celeridad posible porque somos conscientes del tiempo que falta para concluir la legislatura

que nos impone el régimen establecido para la evaluación de disposiciones de carácter general

una irresponsabilidad por mi parte para fijar

pero insisto en que estamos trabajando con mucho rigor con mucha intensidad con mucha celeridad y haciendo un esfuerzo de incorporación del máximo de enmiendas posibles para que sea

sí gracias presidenta egun on guztioi la apuesta

ha sido y es como se puso de manifiesto en la última cumbre aquitania euskadi un asunto de trascendental importancia para el gobierno vasco usted lehendakari junto con el señor rousset el mes pasado su apuesta por unir euskadi y aquitania con el tren de alta velocidad en la última reunión anual de la eurorregión volvió a reconocer lo prioritario que es

paralelamente las obras del tren de alta velocidad en euskadi siguen avanzando y el gobierno de españa mantiene con determinación sus planes y compromisos

plazos y ritmos que solo podrían ponerse en riesgo si cambiaran a corto y medio plazo la configuración política del gobierno de españa

la convicción de que el corredor lisboa madrid parís helsinki sería de máximo interés está muy interiorizado en el seno de la unión europea

pero lamentablemente se ciernen amenazas en forma de retractores y discursos el valor

de la alta velocidad en francia me llevan a preguntarles señor lehendakari en qué están consistiendo sus gestiones y las de su gobierno más allá de las declaraciones públicas recordando la prioridad de la conexión ferroviaria de alta velocidad con francia

legebiltzarkideok sí señora ruiz efectivamente como usted sabe estamos muy ocupados en la

y también en impulsar en todos los lugares en los que tenemos voz el resto de tramos tanto los que está realizando el gobierno español como

en el marco de la unión europea por enmarcar

de todos es conocida estamos ante uno de los nueve corredores definidos en el reglamento de la unión europea del parlamento europeo y del consejo

para el desarrollo de la red transeuropea de transporte una y otra vez europa nos recuerda

uno de los nueve corredores fundamentales y estratégicos de la unión ya en el

insistiéndole y haciéndole ver esta necesidad esta prioridad de esta red en un momento en el que el gobierno español

con sus tramos el presidente rajoy contestó el

ratificándose en la importancia de la red y en la importancia de estos tramos pero sin poner en marcha ninguno de los mecanismos que eran necesarios en aquel momento para poder haber llegado en unos plazos

como en las reuniones bilaterales con el gobierno español y en este momento parece ser que el gobierno español está llevando a cabo los trámites necesarios

compromiso de dos mil diecinueve que dijo la ministra ana pastor pero es que aparte de esa carta al señor rajoy también en cada una de las

siempre insistimos y siempre se hacen manifestaciones en ese sentido porque el gobierno vasco y el consejo regional de aquitania trabajamos en colaboración en la eurorregión y pedimos recurrentemente tanto al estado español como al estado francés que cumplan con este compromiso europeo para construir y poner en servicio el corredor

además de todo eso como es una red europea y es una red prioritaria europea también trabajamos en el parlamento europeo trabajamos en el parlamento europeo a través de nuestra europarlamentaria

tuvimos una visita de la comisión de transportes del parlamento europeo con el señor cramer a la cabeza de los grandes alemanes donde también el señor cramer hizo un aviso de europa a francia para que cumpla el compromiso
y de continuidad a esta y eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea

sí gracias de nuevo presidenta pues me ha sorprendido un poco la respuesta además máxime cuando

no era malintencionada realmente lo que quiero saber es qué gestiones se están haciendo más allá de declaraciones públicas cuando se reúne la eurorregión y el lehendakari urkullu y el señor rousset hacen declaraciones reivindicativas

qué gestiones y me habla de la carta a rajoy

la duda sobre la determinación del gobierno español yo creo que está más que de sobra descartada

ya digo que me deja un poco decepcionada la respuesta

ha mezclado las gestiones del gobierno y preguntaba además concretamente las gestiones del señor lehendakari y me habla de su parlamentaria entiendo que me está hablando de la señora bilbao y de la visita que hubo aquí en el país vasco yo creo que está

equivocando planos yo lo que sí que he visto es que se está restando importancia

y se está reformulando el discurso sobre el tav que pudiera resumirse en unas palabras que se dijo es bueno en sí mismo

más importante a nuestro entender insistir en ese discurso creo que resta fortaleza a las acciones y gestiones que

para que realmente nuestros intereses estratégicos vayan adelante pocas veces he escuchado en esta

como gobierno vasco y simplemente hablar

como en el parlamento europeo por eso creo que

independientemente de lo que pase en francia eskerrik asko ruiz andrea

sí efectivamente el lehendakari ha pedido reiteradamente

que en las cumbres que se dan entre los estados francés y español donde se trata

gasteiz dax se haga hincapié en estas cuestiones y también reiteradamente en las reuniones que se tienen

las bilaterales que puede tener con el embajador con la embajada francesa también se reitera insistentemente el lehendakari personalmente reitera insistentemente esta

lehendakari consejeros y consejeras buenos días bien un error ha llevado a

que rectificar pedir disculpas por la consideración de grupo terrorista que durante un tiempo se ha producido en relación

gobierno vasco covite la asociación vasca de víctimas del terrorismo se dio cuenta denunció esa

que se movieran en la secretaría general del señor fernández esta cuestión un desafortunado error podía haber sido menor de no ser por esa actitud de hostilidad y crítica encendida que despliega el departamento

de la policía y sus máximos responsables hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado es un clima el que hay que además se nutre

errores asimismo el gobierno pues está siendo incapaz de enfocar una relación normalizada realista con los colectivos de víctimas del terrorismo y meteduras de pata

no ayudan a ese clima a esa normalización usted lehendakari es

el departamento de presidencia lehendakaritza y se adscribe la actividad

y en ese sentido yo creo que se hace necesario no solamente una nota de prensa en relación con esa cuestión

la expectación que suscitó ese error por otro lado y algunas declaraciones de algunos colectivos afectados

sin duda en el marco luego de las disculpas y del reconocimiento del error pero yo

que por su parte se den aquí las explicaciones oportunas y en ese sentido le preguntábamos si considera que este incidente

depurando responsabilidades por el daño causado

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztioi dejando a un lado señor barrio

lectura íntegra de lo que es la justificación de su pregunta ha reiterado en su intervención usted mismo califica como error desafortunado este incidente cuyo origen es ajeno al gobierno vasco señor barrio y usted lo sabe mire

a la directora de víctimas y derechos humanos de la secretaría general de paz y convivencia por la empresa responsable de la actualización de la página web y la nota enviada dice así literalmente en primer lugar pedir mil disculpas por lo sucedido estoy totalmente superado por la situación

en el que no tuvimos en cuenta que se podía publicar el menú solo me queda asumir mi responsabilidad y ponerme a vuestra disposición para dar las explicaciones pertinentes

esta es la nota de la empresa a la directora de víctimas y derechos humanos el gobierno vasco aceptó las explicaciones y también las disculpas presentadas

a covite a quien usted ha mencionado y a otras asociaciones de víctimas el gobierno emitió una nota reconociendo el error cometido y pidiendo disculpas de forma pública el ministerio y las asociaciones de víctimas

aceptando que se trataba de un error involuntario y que no hubo intencionalidad alguna usted mismo conoce esto que le estoy respondiendo señor barrio

desafortunado como también insisto usted lo menciona y no es inducido ni mucho menos por el gobierno vasco el error se subsanó de inmediato se reconoció

esto señor barrio es asumir la responsabilidad de forma proporcional a la realidad de este caso originada por una empresa ajena al gobierno vasco eskerrik asko

gracias presidenta sí yo tengo que agradecer al señor lehendakari desde luego el reconocimiento del error y el valorar que

y que hubo que pedir disculpas es una pena la verdad que es una pena que muchas veces en vez de

reconocimientos en vez de agradecimientos por su labor pues

en las críticas en los insultos y en los errores esa es una pena desde luego bueno el gobierno yo también hablé con el señor fernández

sucedió lo que sucedió y bueno ya dio las explicaciones pero yo creo que era bueno que usted compareciese en el parlamento y reconociese ese error

y que entiendo que se compromete a que se tomarán

empresa para que estas cuestiones en temas tan comprometidos y tan no se vuelvan a producir porque no es justo ni siquiera por errores no es justo ese tratamiento que a veces es reiterado es decir yo la verdad es que me ha gustado una cosa tras el incidente la asociación unificada de la guardia civil

a celebrar un acto de reconocimiento que se merece la labor tan importante de la guardia civil en el país vasco reconozcamos que han perdido la vida

señor barrio yo agradecería que no mezclara las críticas que podemos hacer a la gestión del ministerio de interior y en la relación con el departamento de seguridad introduciendo en esta crítica a la guardia civil como fuerza y cuerpo de seguridad del estado

junto con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado yo le invito a que mire en la hemeroteca también de lo que son las decisiones del parlamento vasco

reconocimientos en los que yo mismo he participado yo sigo insistiendo después del reconocimiento del error por parte de la empresa en que estamos ante un nuevo tiempo y que deberíamos estar todos los grupos en la línea de la colaboración no puedo entender que se siga queriendo mezclar cuando

en la justificación de su pregunta que sigamos en lo que pueda ser la intencionalidad en lo que yo entiendo que son los juicios de valor

del terrorismo insisto que a covite también como a otras asociaciones de víctimas se le dieron las explicaciones pertinentes y así fueron aceptadas

para propiciar el entendimiento y fortalecer la convivencia en euskadi y no será por lo tanto que este gobierno acepte lo que pueda ser una intencionalidad en un error reconocido por la propia empresa y que insisto está dispuesta a dar las explicaciones

buruz maneiro jauna zurea da hitza sí gracias presidenta es la misma pregunta señor lehendakari efectivamente
covite denunció el hecho de que el gobierno vasco incluyese a la guardia civil en un listado de grupos terroristas dentro de la web

datos relativos a las víctimas del terrorismo en fin consideramos que es un hecho flagrante me parece que es un hecho ciertamente lamentable y creo que no se puede trasladar la idea de que la responsabilidad es de una empresa privada creo que es

usted no únicamente a decir que este es un error informático creo que no debe quedarse ahí debe decir que

no solamente a covite o a las víctimas de terrorismo sino al conjunto de la sociedad y a la guardia civil

yo creo que esto es lo que debería decir pedir perdón públicamente al conjunto de la sociedad asumir su responsabilidad

y efectivamente creo que también usted debería agradecer y poner en valor a la guardia civil creo que este parlamento no se ha posicionado en esos términos en los últimos tiempos de manera lo suficientemente contundente no ha habido un homenaje en esta cámara de defensa de la guardia civil y de la trayectoria de la guardia civil en su lucha contra el terrorismo no lo ha habido no lo ha habido lo suficientemente claro yo al menos no lo recuerdo y creo que usted debería aprovechar esta oportunidad para hacerlo señor lehendakari la guardia civil ha sido la organización que más ha luchado contra eta durante años estaría bien que usted

esta ocasión para decirlo para reconocerlo que la guardia civil ha sido el cuerpo de seguridad que más ha luchado contra eta durante años creo que usted debería decir que la guardia civil ha realizado una labor extraordinaria que nunca podremos agradecer suficientemente creo que podría aprovechar este asunto para decirlo y se lo agradeceríamos muchísimas personas covite

y miles y miles de ciudadanos podría aprovechar este asunto para decirlo quedo a la espera de que usted lo diga

cuántos guardias civiles han sido asesinados por eta durante las últimas décadas sabe cuántos

puede aprovechar esta oportunidad no únicamente para decir que ha sido un error informático no solamente incluso para pedir disculpas no solamente para decir que esto no va a volver a repetirse

su extraordinario trabajo en defensa de las libertades y en su lucha contra eta hágalo por favor eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado sea policía nacional guardia civil como incluida también la ertzaintza

lo hice como también he hecho este reconocimiento personalmente a las víctimas del terrorismo en mis encuentros con víctimas del terrorismo en el pasado y espero seguir manteniendo en el presente y en el futuro pero creo que ante lo que es su planteamiento ha

también en este caso y la realidad es que se trata de un error informático

reconocido y pedido disculpas mire señor maneiro por si usted no lo sabe

un guardia civil mató a un policía nacional al confundirle como miembro de eta

a la guardia civil en su conjunto en el campo de la autoría además la empresa pública

antes de la supervisión por parte del gobierno un error evidente yo considero suficiente la explicación de la empresa que ha cometido un error involuntario

pudo comprobar la inmediata reacción del gobierno vasco como también el ministerio del interior y aceptó las explicaciones recibidas la explicación creo que ya es suficiente

a las propias asociaciones de víctimas y a covite en particular y que puede ser entendida por lo tanto por

insisto en que las explicaciones han sido entendidas aceptadas y agradecidas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

sí gracias lehendakari no me voy a extender únicamente quiero decirle dos cosas por un lado quiero pedirle que esto no vuelva a ocurrir

están muy sensibilizadas están muy afectadas

hagan todo lo posible para que este tipo de entre comillas errores informáticos no vuelvan a ocurrir y por favor señor lehendakari sea usted más claro en relación a su pronunciamiento en relación al trabajo realizado por la guardia civil durante todos estos años sea más claro porque este parlamento no lo ha sido y su grupo político no lo ha sido al menos durante los últimos seis años por lo tanto sea más claro diga que la guardia civil merece todo su reconocimiento

en contra de eta es una labor absolutamente extraordinaria que nunca agradeceremos suficientemente creo que usted podría utilizar estas mismas palabras

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor maneiro usted en determinadas cuestiones

de este parlamento y más particularmente en lo que son los pronunciamientos del grupo parlamentario nacionalistas vascos falta permanentemente a la verdad

gertatutakoa argitu eta barkamena eskatu egin zuen cometer errores es humano como es humano admitirlos corregirlos y disculparse por ello lo que no es ético señor maneiro es utilizar a las víctimas como bandera de agitación y confrontación permanente sería bueno que usted también

lo que es la verdadera relación de este gobierno vasco con las víctimas del terrorismo espero que en el inmediato futuro pueda usted tener prueba de ello si hasta ahora no ha querido asumir que esta es la realidad en la relación de este gobierno para con las víctimas usted se empeña en acusar permanentemente al gobierno de falta de respeto a las víctimas incluso cuando la propia covite aceptó nuestras explicaciones y disculpas

el alejamiento entre víctimas y sociedad la distancia entre víctimas e instituciones y particularmente entre las víctimas y el gobierno vasco nuestro empeño mi empeño personal y de mi gobierno va a seguir siendo promover la unidad y la confluencia fortalecer una cultura en la paz y en la convivencia por encima de sus juicios de valor

gallastegui anderea zurea da hitza muy bien muchas gracias presidenta
buenos días señorías señor lehendakari consejeros bien

el gobierno pise la realidad y para que subsane esa falta de cintura para entender el sentir mayoritario de este parlamento a la hora de legislar porque justo antes de la campaña en una fecha que el propio gobierno eligió porque es quién marca sus ritmos y envío de leyes se encontró con la obligación de devolver la ley de administración pública vasca

pero en nuestro caso y yo creo que lo sabe usted señor erkoreka prácticamente desde el principio

podría haber sido y de hecho así fue rechazada porque no abordaba ni la ordenación del sector público ni apostaba por la transparencia radical que reclaman los ciudadanos

trabajamos cada artículo y presentamos a parte de nuestra enmienda de totalidad añadimos un centenar de enmiendas que apuntan por donde puede ir mejorarla

el gobierno sustrajo la confrontación democrática de opiniones en el parlamento a una hora de iniciar el debate leídas las tres enmiendas de totalidad efectivamente como el estudio dice las tres como decía el señor maneiro entre las tres las coincidencias está

entre otras cosas la ley debiera dividirse en dos leyes una sobre el sector público y otra estricta sobre transparencia después

a aceptar de una tacada un montón de enmiendas porque según dijo compartía muchas aportaciones si lo que dijo es verdad

pocas veces tendrá tan fácil esté gobierno poder sacar adelante una ley nos gustaría pensar que han aprovechado estas cinco semanas y como le he oído atentamente las respuestas que daba la interpelación del señor maneiro pero no me ha quedado muy claro le preguntamos

para regular el sector público vasco y la transparencia incluyendo las aportaciones
realizadas por los grupos hace dos meses eskerrik asko gallastegui anderea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

señora gallastegui como creo que he dejado bastante claro al final de mi intervención

en la interpelación presentada por el señor maneiro creo que esta cuestión ya no merece la pena ni tiene sentido abordarla desde una perspectiva retrospectiva

lo que ahora interesa y lo que nos piden los ciudadanos y ciudadanas es que lo abordamos

desde un punto de vista prospectivo y a ser posible proactivo y constructivo por parte de todos y ese es el ánimo

con este proyecto de ley que ahora está ya trabajándose en el gobierno como

era compartido por los grupos parlamentarios que representan la mayoría usted me pregunta por la fecha en la que

como he anticipado en la intervención anterior me resulta un poco complicado definir esa fecha pero le voy a dar una respuesta a una pregunta que creo yo que es mucho más operativa en este momento cuándo

consejero y su equipo están dispuestos a reunirse con usted para hablar de esos dos proyectos de ley anteproyectos todavía para negociarlos para compartirlos en la medida de lo posible y presentarlos en la cámara de la manera más consensuada posible la respuesta es clara inmediatamente no le voy a invitar a reunirnos mañana porque es sábado y juego el athletic pero la semana que viene me pone usted día y hora

me alegra muchísimo tener noticias buenísimas en ese sentido ahora le recuerdo que el athletic juega por la tarde quiero decir que podemos trabajar por la mañana

lo que sí el digo es que efectivamente me parece muy bien la posición del

nosotros como grupo también preferimos quedarnos con el compromiso ese que adquirió usted a renglón seguido del rechazo del proyecto de ley y

más de seiscientos veinticinco enmiendas que se aportaron y que pueden enriquecer de una manera muy importante ambos proyectos desde luego

en múltiples ocasiones que si nos quiere encontrar para iniciar la tramitación de cualquier ley que sea buena y que

no solamente con estas sino cualquiera de las leyes que desde cualquier departamento del gobierno se pretendan traer al parlamento para su aprobación y yo creo que de todo se aprende y de los errores se aprende y en ese sentido pues he de felicitarle porque

lo hubiéramos hecho antes no es una cuestión de echar la vista atrás

avanzado muchísimo podríamos tener incluso ya aprobada una ley que regulara el sector público vasco y

en cualquier caso yo le tomo la palabra y fijamos día y hora para
hablar de esta cuestión eskerrik asko erkoreka jauna

barrio jauna zurea da hitza muchas gracias

consejeros consejeras vamos a cambiar el fútbol por la pelota

vamos a hablar de la pelota vasca y bueno de sus necesidades que también es importante yo creo hablar de eso

once de junio del deporte del país vasco contemplaba una cuestión referente una cuestión importante que tuvo su andadura y su desarrollo pero que

que se puede retomar con el fin de impulsar hablaba

aprobará en el plazo de un año un plan estratégico dicho plan

vascas implicadas el consejo vasco del deporte y demás agentes relacionados con dichas modalidades hablaba de una serie de cuestiones en relación con esos planes estratégicos

objetivos del plan medidas para la consecución de dicho objetivos en concreto

plazos de ejecución de plan procedimientos y plazos para la revisión del plan

una serie de cuestiones para el impulso para la consolidación para el desarrollo para la reorientación

del deporte de la pelota vasca en sus modalidades yo creo que es un buen momento para pensar en reproducir algo así a día de hoy en ejecución de dicha ley y del plan vasco del deporte dos mil tres dos mil siete se elaboró ese plan estratégico de la pelota vasca dos mil seis dos mil diez dicho plan marcaba

que correspondía realizar a los agentes implicado en su ejecución es decir y bueno ahí están muchos de ellos son conocidos

determinados protagonismos la federación de pelota vasca de euskadi el consejo mundial de la pelota vasca

con la administración por supuesto llamados a desarrollar acciones contempladas en el plan y en ese sentido subvencionados para tal fin en los respectivos acuerdos

de comprobarlo y de verlo en diferentes presupuestos del gobierno en relación con los distintos planes estratégicos mencionados

se describen esas relaciones

de ese plan estratégico lo cierto es que la cuestión pues vuelve a ponerse de actualidad en cuanto a la necesidad una reciente comparecencia quiero decir que yo voy a hablar y voy a entrar en la cuestión de lo que es el plan estratégico no voy a entrar

en relación con desencuentros federativos y algunas acusaciones realizadas bueno hubo una comparecencia estamos a la espera

de nuevas comparecencias en el parlamento del presidente del consejo mundial de pelota o del propio director de deportes del gobierno vasco para valorar esos desencuentros yo no quiero entrar en esas cuestiones sí

a lo que me refiero a lo que es el plan estratégico y la necesidad de potenciación

como el de la pelota que dicho por sus federativos por los que viven todo el día ese deporte desde dentro está en crisis y vuelvo a decir esa reciente comparecencia de responsables federativos en la comisión de cultura y deporte del parlamento vasco puso de manifiesto

entre otras cuestiones que se abordarán en el momento oportuno vuelvo a decir la necesidad de realizar un nuevo plan estratégico ante la consideración y decían

que vive la pelota vasca en sus distintas modalidades ellos se referían más concretamente a algunas de ellas a la cesta al remonte a la pala más concretamente a esas pero

con el deporte de la pelota vasca y sus modalidades decían situación crítica y eso pues llama la atención eso pone luces de alarma

los responsables federativos pues también hablaban de la necesidad de lograr un diagnóstico certero de la situación actual en la que tenían que participar todos los agentes implicados es una cuestión importante y desde luego que algo de así realizar a la vista de estas consideraciones y de la necesidad de realizar una reflexión institucional sobre la situación del deporte de la pelota vasca y sus necesidades nosotros es cuando presentamos esta interpelación a la señora consejera de educación

en otras legislaturas ya hemos visto documentos de desarrollo o planes de

recientemente en la anterior legislatura pues la propia consejera

que conocimos que se había tratado en poo en dos mil diez en la asamblea de la federación internacional de pelota vasca en relación con

determinadas claves olímpicas del deporte de la pelota vasca hablaba un informe que se llamaba frontón dos mil veinte pelota vasca deporte olímpico se interrogaba son cuestiones el documento pues es un documento sencillo ahí estaba hacía reflexiones en relación con el desarrollo de ese deporte y desde luego son cuestiones que sirven pero en este momento ese desarrollo o esas

o esos análisis orientados al futuro se encuentran con la situación crítica con la situación de problemática de la pelota vasca y de sus modalidades

con ánimo de entender que podemos trabajar desde las instituciones públicas con el entramado federativo con los propios clubs para hacer algo en favor de salir de esa situación crítica que seguramente lo será en muchos casos por las cuestiones

de forma de entender la práctica de las distintas modalidades deportivas de la pelota vasca entendemos que es bueno

con la potenciación en esta época de crisis deportiva de la pelota vasca sobre la base de la consideración que un nuevo plan estratégico

a impulsar por el ejecutivo en cumplimiento de la citada disposición adicional quinta a la que me he referido antes vuelvo a decir ese plan puso en su momento

la federación vasca con otros ámbitos incluso educativos que usted bien conoce y en ese sentido

cómo valora esta petición que puede ser nuestra si la convertimos en moción pero que ya es de la federación vasca de pelota que

bai kirola orokorrean eta baita euskal pilota ere el deporte es estratégico en el desarrollo armónico de la sociedad juega una función importante en el ámbito educativo

y por ello son numerosas las actuaciones que se están llevando a cabo desde la dirección de juventud y deportes para promocionar e impulsar un modelo deportivo vasco referente y de calidad para el siglo veintiuno sé además que usted conoce bien la actividad que se está llevando a cabo

que se llevan a cabo en torno al ámbito deportivo en el seno de la comisión de cultura euskera juventud y deporte en el ámbito del deporte entre nuestros ejes estratégicos destaca el destinado a diseñar un plan estratégico de gobierno para que euskadi sea referente en la actividad física que realice su ciudadanía dicho plan

ya ha sido presentado ante este parlamento queremos realizar con ello un cambio cultural y social para que la actividad física sea sinónimo de salud

queremos fomentar la actividad física desde la infancia con el objeto de evitar la obesidad infantil horiexek dira gure ildo estrategikoak baina baditugu beste ardatz batzuk ere

por tanto este gobierno ya ha comunicado a la federación vasca de pelota y al consejo mundial de pelota su intención de llevar a cabo un plan estratégico

tanto fue así que la propia federación vasca de pelota no dudó ni un segundo en anunciarlo ante la comisión de cultura euskera juventud y deportes

lo importante es que todos estamos de acuerdo en la necesidad de elaborar dicho plan de este modo es nuestra intención comenzar próximamente la necesaria tramitación para que podamos comenzar la elaboración de dicho plan estratégico a partir de septiembre y se prevé que pueda estar concluido a final de verano de dos mil dieciséis

en la ocasión anterior se pretende llevar a cabo una fase previa de recogida de información cuantitativa a través de federaciones clubes ayuntamientos y diputaciones para después realizar entrevistas a expertos y a agentes que operan en el sector

con el objeto de conocer la situación real de la pelota vasca en euskadi y crear un buen diagnóstico de situación que nos permita identificar las debilidades

las fortalezas y las oportunidades para posteriormente reflexionar y desarrollar una estrategia de futuro para realizar el diagnóstico de la situación actual de la pelota vasca se analizará cada uno de los cuatro niveles de práctica deportiva en los que se divide el modelo deportivo vasco

deporte escolar deporte de participación deporte de rendimiento y deporte de alto rendimiento euskal pilotaren egoeraren azterketa sakon horrek

gracias señora consejera me alegro de que compartamos

y el hecho de que hay que trabajar en relación con la elaboración de ese plan estratégico reclamado en relación con la situación crítica que comentaban los responsables de la federación vasca de pelota el hecho de ser un marco idóneo para realizar ese diagnóstico certero en relación con la situación actual efectivamente eso es así y por eso mismo nuestra moción yo creo que ayudará a enfocar el tema a que desde el parlamento también importancia a la cuestión en relación con el plan estratégico y hacer en torno a la moción que anunciamos en consecuencia de esta interpelación pues un debate público que yo creo que será constructivo y de referencia pues para poder sentar las bases de ese nuevo plan estratégico de alumbrado y por eso mismo

es importante está claro que se hablaba de aspectos económicos efectivamente ahí están el descenso tan importante de los fondos económicos en deporte durante estos años pero siendo esto así ahora que se puede recuperar

de realizar los compromisos de futuro si no lo hacemos nosotros no lo hará nadie en relación con estas cuestiones

cultura deportiva de nuestras señas de identidad y en ese sentido no vendrá una reordenación de ese deporte si no lo hacemos nosotros en otras disciplinas pues ya sabemos

o no es nadie y entonces es la situación crítica ya puede ser situación letal

el modelo deportivo vasco exacto eso es lo que la pelota es significa y

nosotros que realizar el plan estratégico además va a ser y debe ser

complejo y complicado y problemático entramado federativo en relación con la pelota vasca con complicaciones y con problemas y con desencuentros puede ser la elaboración el enfoque el planteamiento de ese plan estratégico un ámbito

para superar precisamente esos desencuentros detectados

analizando en este parlamento o sea que además de ser de promocionar el deporte de la pelota vasca

y a su renovación no cabe duda de que esto tiene que ser así también

debe tener una cualidad especial este plan estratégico no solamente el aspecto puramente cuantitativo deportivo sino que también tiene que tener un ámbito un aspecto una importancia un nexo de unión un ámbito de encuentro de un mundo

con problemas con muchas desconfianzas con muchas

vayan bien es necesario unificar criterios es necesario unificar actitudes y es necesario más confianza es necesario menos personalismo y eso desde luego podrá establecerlo un plan estratégico de estas características podrá ser un ámbito de encuentro podrá serlo esperemos que sea así pero efectivamente además

para promocionar el deporte de la pelota vasca es necesario cuestiones importantes en ese plan estratégico es la redimensión de las modalidades de la que siempre se habla pero bueno parece que no se puede hacer nada de momento la implicación de agentes y clubes en ese ámbito de encuentro la redimensión federativa

lo que tiene que ver con las profesiones deportivas en estas cuestiones de las que también tendremos que hablar en algún momento en esta legislatura esas son cuestiones fundamentales

trabajar en esta línea que algunos entendemos necesaria y que

lo más constructivo posible y ayudar al gobierno a esa labor en los próximos tiempos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

es nuestra intención elaborar un nuevo plan estratégico de la pelota vasca que recoja de manera sistemática y estructurada las medidas necesarias para impulsar el desarrollo de dicho modalidad deportiva

dicho documento deberá responder a los siguientes objetivos conocer la situación actual de la pelota vasca en euskadi identificar los próximos desafíos y oportunidades para dar respuesta a los mismos reflexionar y desarrollar una estrategia de futuro participativa identificar objetivos y líneas estratégicas y determinar acciones y proyectos que permitan la consecución de las líneas estratégicas definidas

se considera fundamental la puesta en marcha de una comisión de seguimiento

todo ello con el objetivo principal de promocionar la pelota vasca en sus diferentes modalidades y en los diferentes segmentos de la práctica deportiva besterik ez

gracias presidenta consejera

enmarcar para informarnos son tres en su departamento son cuatro pero uno es más del ámbito educativo

para este año dos mil quince el proyecto de ley de documentos y archivos de euskadi

en el presente semestre y los de patrimonio cultural del país vasco

porque es importante porque también conocemos la problemática el del ejercicio de las profesiones de deporte del país vasco

hemos podido constatar que de las previsiones iníciales pues alguno de los proyectos pues parece que se ha ido retrasando el

en su fecha de entrega al parlamento y consideramos nosotros que

que es necesario porque lo hemos visto en muchas cuestiones cuestiones puntuales cuando hemos hablado de determinados monumentos o de calificaciones

pero que es necesario desde luego un instrumento legal en este caso normativo más eficaz y actualizado modernizado para la defensa de nuestro patrimonio cultural se ha demostrado insuficiente lo que tenemos y en ese sentido

así mismo así mismo se demuestra de gran importancia porque detectamos que los profesionales del deporte necesitan más seguridades y hay un ámbito todavía de actuación importante el proyecto de ley de

que operan en el mundo del deporte son cuestiones importantes relevantes son tres proyectos de ley no están todavía en esta cámara se han retrasado alguno de ello alguno tiene que estar

en qué estado de situación se encuentran los borradores de los proyectos de ley aludidos de cara a que puedan ser aprobados

lo que entre probablemente más tarde del verano

en ese sentido en esos tres proyectos de ley cuál es la situación porque consideramos importante trabajar sobre esos instrumentos jurídicos muchas gracias

se trata por tanto de una herramienta abierta y flexible y de transparencia que permite realizar un seguimiento a la planificación y actuación normativa del gobierno de hecho cada seis meses se realiza un documento de seguimiento del mismo

además a través de la página web se informa puntualmente del avance de los proyectos legislativos de los planes gubernamentales y de los planes departamentales en todo caso señor barrio ya que me pregunta usted por el estado de situación en que se encuentran los proyectos de ley que este departamento está tramitando en el ámbito de la cultura y el deporte

por tanto es nuestra intención remitir dichos proyectos de ley a consejo de gobierno en este presente ejercicio eskerrik asko uriarte andrea barrio jauna zurea da hitza

gracias presidenta vuelvo a decir

en esta legislatura porque o sea que bien está previsto uno de ellos de archivos

muy necesario para la ordenación de nuestro patrimonio y el de profesiones deportivas así que yo le pediría que no se retrase a finales de año que sea en septiembre a poder ser cuando lleguen esos proyectos de ley porque a partir de octubre como usted bien sabe entramos en los presupuestos todo se ralentiza todo se retrasa todo se paraliza

y el de profesiones deportivas que necesitamos que se integren cuanto antes ustedes mismos dicen que ámbito del patrimonio cultural es necesario una concepción más amplia del patrimonio cultural un instrumento normativo actualizado completo y sistematizado y en lo que afecta al deporte también

bi mila hamabosteko bigarren seihilekoan bidali ahal izango dugu gobernu kontseilura la ley de documentos y archivos del país vasco

y de archivos así como para la creación del archivo histórico de euskadi una vez finalizado el trámite de audiencia e información pública se ha procedido a incorporar las modificaciones pertinentes se procurará que este proyecto de ley pueda elevarse a consejo de gobierno en este mes de junio azkenik